señora consejera estamos preocupados porque les conocemos porque sabemos cómo se las gastan porque conocemos su historia

y no creemos en el adoctrinamiento ideológico por eso estamos preocupados efectivamente no han inventado nada esto no es nuevo esto es más esto es lo que han hecho esta es su historia este es su bagaje este es su pasado

ideológico y la imposición de una determinada forma de ser vasco y efectivamente ustedes son así ustedes son nacionalistas y por lo tanto tendrán

tenemos mucho interés efectivamente y estamos muy preocupados porque les conocemos pero ya digo que el resultado no va a ser satisfactorio para todos eso también se lo digo no puede ser satisfactorio para todos

o satisface a los que defienden el adoctrinamiento ideológico y la imposición así de sencillo habrá que elegir igual nos sorprenden y eligen

igual nos sorprenden pero sería una gran sorpresa ojala puedan dárnosla lo que nos queda

y seguir diciendo que lo que hay que defender es la mejor educación posible educación pública educación laica educación en valores ningún tipo de adoctrinamiento ideológico ni imposición eso es lo que hay que defender vamos a intentar

entre algunos convencemos al gobierno vasco para que actúe de ese modo pero es complicado eskerrik asko maneiro jauna

no estamos aún en fase de redactar un nuevo currículum tal y como he manifestado en mis anteriores intervenciones

se está trabajando un acuerdo una planificación que dé respuesta a la necesidad de consolidar un sistema educativo que garantice la mejora educativa

un plan en el que todos los agentes educativos están formando parte

sino todos los agentes educativos con independencia de ideología y con independencia de su posición eusko jaurlaritza hezkuntza eragileekin

ari gara kolore eta margo anitzeko jendearekin en cualquier caso quisiera llamar la atención sobre un término que he repetido hoy una y otra vez

todo nuestro planteamiento consenso adostasuna acuerdo

usted mismo afirma de su justificación que proponemos elaborar y consensuar un marco de modelo educativo propio del currículum vasco elaborar

los decretos normativos del gobierno efectivamente estamos trabajando para elaborar y consensuar un marco pedagógico que garantice la mejora educativa

sí señora consejera el famoso consenso consenso

muchos disparates ese es problema no basta con apelar al consenso hay que hacer

bien y ya digo hay que defender la pluralidad la diversidad de pensamiento la educación laica la mejor educación posible

que no adoctrine ideológicamente yo creo que se va a plantear lo que ustedes han venido planteando históricamente

algunos pequeños cambios habidos en la legislatura anterior esto lo conocemos bien vivimos aquí

lo que ustedes se plantean es una pretensión nacionalista y que se prepara una operación política con objetivos políticos una nueva vuelta de tuerca

ideológico para la defensa de la identidad uniforme del pueblo vasco para defender la gran euskal herria para inocular manipulaciones históricas

de producir más ciudadanos nacionalistas esto es lo que ustedes han hecho y nosotros nosotros estaremos en contra y lo denunciaremos porque creemos en la libertad creemos en la libertad y cuando digo

a una gran parte de la sociedad vasca que cree en la libertad y que está en contra de adoctrinar y que hay que

mirar al exterior no tratar de intentar convencernos de que somos

creo que es lo que ustedes van a hacer porque es lo que ustedes han hecho y nosotros intentaremos que ustedes no puedan hacer eso esa es la posición política de upyd

señor maneiro yo creo que la pluralidad existe en el sistema de educación si no me equivoco existe en el sistema de educación si nosotros buscamos el consenso y el acuerdo

damos por supuesto que esa pluralidad va a existir y eso será beneficioso para todos eso es lo que nosotros estamos proponiendo

el consenso el acuerdo de todo el sistema de educación y de todos los agentes lo he dicho una

habla usted de adoctrinamiento ideológico es más

un adoctrinamiento ideológico de los jóvenes vascos para convertirlos a todos en nacionalistas vascos en base a qué llega usted a dicha conclusión de verdad que usted ha llegado a esta conclusión tras leer la propuesta presentada por los agentes educativos o por lo que ha salido en prensa

alguno de los agentes educativos hubiera protestado gauza bat azpimarratuko dizut hezkuntza lehentasuna da gobernu honentzat

el pasado veinte de septiembre este parlamento adoptó por decisión de todos los grupos excepto el que apoya al gobierno el siguiente acuerdo el parlamento vasco insta al gobierno vasco a seguir suscribiendo convenios de colaboración

y la universidad del país vasco que garanticen la continuidad de nuevas ediciones del grado en gestión de seguridad y emergencias usted conoce bien este tema

como digo el respaldo de todos los grupos excepto el del pnv porque el problema de quienes estudian el curso de grado en gestión de seguridad y emergencias se lo pusimos sobre la mesa el pasado veinticuatro de mayo aquel día

como de la gestión del mismo defendimos entonces seguir con el planteamiento iniciado por la anterior dirección

se trataba de mantener el convenio de colaboración entre esta entidad y la universidad del país vasco

fórmula que usted rechazó atendiendo a lo que quienes realicen el curso nos plantean este grupo socialista presentó una iniciativa reclamando el convenio que como digo se ha transformado en un mandato político es por lo que le formulo la siguiente pregunta

para seguir suscribiendo convenios de colaboración entre la academia vasca de policía y emergencias y la universidad del país vasco que garanticen la continuidad de nuevas ediciones

exposición de motivos del convenio en cuestión al que usted ha hecho referencia en el punto tercero dice que la finalidad de las titulaciones propias ofertadas por la upv

es entre otras la de ofertar las enseñanzas no establecidas en los planes de estudios oficiales

estableciendo relaciones de colaboración con instituciones y empresas y en el quinto punto de ese mismo convenio dice textualmente corresponde a la academia de policía del país vasco el impulso

de los contenidos y los conocimientos técnicos de los diferentes profesionales avanzando en el desarrollo de las nuevas técnicas y modalidades educativas

pues bien a pesar de esta manifiesta duplicidad de funciones en dos mil once efectivamente firmaron un convenio de colaboración para impartir un grado propio

a impartir en la escuela universitaria de ingeniería técnica de eibar en horario de viernes y sábado un convenio que además ese primer año contaba con una subvención

desde la academia ochenta por ciento del coste total del curso el veinte por ciento restante se financia con las tasas de matrícula

a la propia academia de arkaute o al departamento con treinta y cuatro alumnos todos ellos profesionales de emergencias en activo y para un grado propio que para la upv estaba y sigue estando muy lejos de llegar a ser grado oficial

es verdad la proposición no de ley aprobada recientemente por este parlamento nos insta a continuar con estos convenios

revisaremos pero basándonos en estos mismos criterios eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea unzalu jauna zurea da hitza

gracias señora consejera efectivamente usted me ha contestado lo mismo

el pasado veinticuatro de mayo y en este momento yo creo que ya no es una cuestión no es una cuestión de discutir nuevamente sobre el carácter

ya le he dicho que no estuvimos de acuerdo y seguimos sin estar de acuerdo en los planteamientos de organización y de contenidos y del porqué ese convenio con la upv señora consejera realmente lo que me preocupa porque usted al decir que se revisará no ha dicho que va a cumplir el mandato de esta cámara y realmente me preocupa

en esta sesión de pleno de control que

hace caso omiso a las conclusiones y a las decisiones de esta cámara hace unas horas

nos venía a decir que no va a cumplir un mandato de esta cámara con respecto a la cooperación al desarrollo a los fondos que debe destinar el gobierno vasco a los fondos de desarrollo y usted aquí con decir que va a revisar no nos dice explícitamente que va a respetar y que va

el mandato de esta cámara para mí eso es lo mas importante porque por dos veces que ocurra esto

tenerlo en cuenta y preocuparse de ello porque sabemos el alcance que tienen las proposiciones no de ley y sabemos que ustedes pueden utilizar vericuetos para no cumplirlo y eso está mal pero que se diga expresamente que no se van a cumplir o que no se diga

de cumplir los mandatos parlamentarios me parece que no es darle el valor que debe a esta cámara muchas gracias eskerrik asko

pero no es lo que yo he dicho le he dicho revisaremos la decisión adoptada por respeto a la decisión adoptada en este parlamento y volveremos a analizar con detalle el valor del curso y con los siguientes criterios optimización de los recursos

centro de formación integral de todas las materias también en materia de emergencias porque ustedes además abrieron ese abanico

las expectativas de mercado también hay que analizar cuáles son las expectativas de mercado para las personas que están acudiendo a este curso porque lo que sabemos hasta ahora

los alumnos como he dicho que están acudiendo actualmente a esos cursos son personas que están en activo profesionales

de emergencias y seguridad y la posibilidad también de que sea un grado oficial esta era la perspectiva y el objetivo del convenio es decir valoraremos con la

y por supuesto como ya hemos dicho en otras ocasiones no desdeñamos y no abandonamos la posibilidad de establecer convenios o

de relación con otras entidades con otras instituciones que puedan dar este tipo de formación y que puedan también contribuir a mejorar la formación de nuestros

como nos acaba de recordad la resolución de la dirección general de la cartera básica de servicios y farmacia

resolución a la que hacía referencia al día siguiente este consejero

dejó clara su postura al respecto y manifestamos públicamente que nos parecía una medida injusta y que no pensábamos aplicarla en euskadi además

que presentaríamos en el plazo estipulado un recurso de alzada lo hemos manifestado en repetidas ocasiones estamos en contra del copago en esta ocasión y a en lo que respecta al copago de la farmacia ambulatoria de los hospitales y diríamos lo mismo

defendemos que es una medida injusta y que penaliza a las personas en este caso con enfermedades crónicas graves

estoy de acuerdo no afecta de momento a los pacientes afectados por vih pero podría haber sido vamos a intentar no aplicarlo entre otras razones

desde el inicio de la legislatura que tenemos un compromiso firme con las personas y un compromiso firme con un servicio sanitario público universal y de calidad que tiene entre sus pilares la equidad como así recogimos

de ordenación sanitaria de euskadi en cuanto tuvimos conocimiento de la resolución

para comunicarle nuestra postura y le anunciamos que no lo íbamos a aplicar y que íbamos a recurrir la medida paralelamente

a la señora pilar zarja secretaria general del ministerio manifestando nuestra postura

tanto en el fondo lo fundamental como en las formas de aplicación dado que no aparece de recibo que se nos inste a través de una resolución de un director general del ministerio

con el ministerio cuatro días antes el portavoz del gobierno vasco señor erkoreka se manifestó en el mismo sentido en el primer consejo de gobierno siguiente a la publicación de la resolución y yo mismo acompañado por el director de farmacia ofrecí también una rueda de prensa cuyo contenido

conocen como usted muy bien ha dicho

ha presentado una proposición no de ley para su debate urgente en esta cámara

ha dejar sin efecto esta resolución y también una proposición no de ley en los mismos términos en el congreso de los diputados

de que una solicitud unánime de todos los partidos de esta cámara reforzaría la solicitud del gobierno vasco y dejaría clara la postura de la sociedad vasca

lo que haremos como ya le comuniqué a la ministra es procederemos a presentar un recurso de alzada

por lo tanto lo presentaremos a mediados de este mes solicitando la suspensión

procederemos a acudir al contencioso y solicitaremos la suspensión de la aplicación

respecto a la gestión de la sanidad en euskadi recogida en el estatuto de autonomía de gernika y no estamos dispuestos a permitirlo

llevamos muchos años demostrando nuestro nivel de responsabilidad en la gestión de nuestros recursos propios tenemos voluntad de seguir haciéndolo y estamos convencidos

en lo que a mí respecta es hoy en día lo que es para la sociedad

sisteman esta medida que pretende imponernos el ministerio

y arbitraria a las personas con enfermedades crónicas graves afecta

y en función del tratamiento que elija el médico correspondiente con unos medicamentos pueden copagar y con otros no en la misma enfermedad

una incongruencia clínica que desconcierta a médicos y pacientes uste dugu ministeritzak ez duela neurri hau

irakurri arte para que se hagan ustedes una idea del posible impacto real en las arcas públicas

defender esta medida desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema nacional de salud les voy a explicar lo que supone en términos económicos la aplicación de la medida en euskadi

ha gastado en la farmacia hospitalaria doscientos veintitrés millónes de euros de los cuales el quince coma cinco por ciento del total

es lo que supone el coste anual de los cuarenta y tres fármacos incluidas en la resolución del ministerio y por

del tope marcado en la resolución de esta cantidad recuperaríamos doscientos veinte mil euros el cero coma sesenta y tres

si no del coste de esos cuarenta y tres medicamentos consideramos

al que tendría el necesario refuerzo administrativo de las farmacias hospitalarias

el copago por tanto de la farmacia hospitalaria tal y como se ha planteado no solo es injusto nuestra razón principal si no que tampoco tiene una justificación en aras de la sostenibilidad del sistema sanitario inork ez du ezer irabazten neurriarekin gainera

es el número de comunidades autónomas gobernadas por diferentes políticos que han mostrado su oposición

lamentablemente hoy durante esta mañana que he vuelto a estar en contacto con el ministerio tengo muchas dudas de que la mayor parte de las comunidades

no la vayan a poner en marcha aunque a día de hoy dados los plazos que dieron

probablemente habrá sido imposible por lo tanto señora ubera

frontalmente a cualquier tipo nuevo de copago en el sistema de salud y lo ha hecho hasta donde se lo permiten sus competencias eta horrela

le agradezco la mano tendida siempre nos hacen falta manos para trabajar por lo tanto no se la vamos a rechazar la respuesta del gobierno vasco

nuestra disponibilidad a la hora de gestionarlo no no es lo mismo el copago anterior donde nos opusimos en el congreso de los diputados a la dieciséis barra dos mil doce

y después nos encontramos con decreto del anterior gobierno para intentar limitarlo y recurso ya del tribunal constitucional

no es lo mismo la situación en cualquier caso yo creo que la respuesta y la firmeza del gobierno ante los dos ha sido la misma y probablemente

ante el copago por los diferentes medios gobernua inposaketaren aurre jarri da ez du zalantzarik eduki eta

duzue hori gaur hona etorri baino lehendik el gobierno y el departamento de salud vamos a trabajar por proteger a las personas que servimos llevaremos la firmeza y estudiaremos los recursos y las posibilidades que tenemos para su no aplicación a fecha de hoy como podrá usted conocer

absolutamente nada en ninguno de los hospitales por llevarlo a su aplicación en el decreto que anunció el lehendakari en el pleno de política general y que esperamos que el gobierno lo apruebe en la primera quincena

dadas las fechas que estamos cubriremos también estos cuarenta y tres fármacos por si nuestras resoluciones con el ministerio no llegan a buen punto no obstante dado que me ofrece la mano tendida estamos a escasos días

reclame a las diputaciones forales los datos de la base de renta del año dos mil doce para actualizar el anterior copago

nos parecerá una medida adecuada y así podremos paralizar o dificultar la aplicación del mismo

y si no lo hacen póngase a nuestro lado y no nos exijan a los demás

que ustedes tampoco están en condiciones de asumir no obstante tenga claro que el gobierno con todas sus fuerzas y herramientas a su alcance

y el sistema público sanitario vasco eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

específica de reorganización de servicios este nuevo plan contemplaba un cambio radical respecto al planteamiento del anterior plan funcional de la

digo que un cambio radical ya que en este nuevo plan ustedes hablan de una única organización asistencial de atención a pacientes con patologías agudas en el hua con recursos asistenciales en dos sedes txagorritxu y santiago

cambios sustanciales en la atención hospitalaria en la ciudad de vitoria gasteiz por eso queremos saber si esto es así y en consecuencia si es propósito del gobierno vasco elaborar y presentar un nuevo plan funcional

presentamos el plan funcional del hospital universitario de álava en la comisión de salud

y me dice que ahora se han producido cambios sustanciales en el planteamiento de la atención hospitalaria de vitoria gasteiz quizás

al pacto firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi bien es cierto que en uno de los apartados

hablamos del hua y esperamos ponernos de acuerdo

textualmente el apartado al que entiendo que hace referencia de la presentar

y su plan director de reforma y ampliación agrupando las camas para la atención de crónicos

en el hospital de santiago junto a otras prestaciones asistenciales establecer

del plan director que excederá a la presente legislatura

remarcó en su comparecencia en la comisión de salud y consumo el carácter dinámico y abierto del plan funcional que presentaba y dijo textualmente este plan no termina ni se cierra aquí probablemente se estará ajustando siempre hasta que finalicen las obras de ampliación del hua presentamos también el borrador

a los grupos parlamentarios al ayuntamiento de vitoria gasteiz a la diputación foral de álava y lo presentamos en los dos centros hospitalarios

tanto a sus consejos técnicos como a las juntas de personal

tanto médicos como quirúrgicos si no recuerdo mal y tendrá tiempo de corregirme usted misma alabó en esta comisión el carácter dinámico y abierto del plan y considera imprescindible que este estuviera abierto a sugerencias y propuestas de cambio que

sugeridos se han recogido por lo tanto le contesto afirmativamente a su pregunta sí

todas aquellas modificaciones que se estimen pueden mejorar la asistencia sanitaria

la incorporación de nuevas tecnologías que precisen sus profesionales

para esta legislatura el pasado día dieciocho de febrero ante la comisión de salud y consumo vera que la postura actual del proyecto

gracias señora presidenta bueno sí había hecho referencia a la adenda en mi justificación pero por esas cuestiones de tiempo

en definitiva nuevo plan funcional señor consejero respecto al presentado el pasado veintidós de mayo y todo apunta a una rectificación

intención inicial que tenía este gobierno y hay que recordar que los principales jefes de servicios del hospital de txagorritxu que comparecieron también en la comisión de salud y consumo

concretamente el reparto de especialidades entre los dos centros separando especialidades que chocaban con la idea de impulsar claramente un modelo integral de atención

pusimos de manifiesto que seguía sin darse una respuesta suficiente a la problemática

en la ciudad de vitoria gasteiz y también se puso énfasis en esa comisión y por los distintos responsables de las distintas especialidades que vinieron a la comisión

tanto como pacientes y de profesionales que acarreaba el plan que ustedes presentaron aquí el veintidós de mayo por lo tanto podemos decir que el modelo suyo estaba claramente cuestionado

pueda ser dinámico y un borrador obviamente puede ser objeto de cambios usted está hablando aquí de un nuevo modelo

yo lo que sí le quiero decir es que el partido popular una vez más y desde esta tribuna reclama que ustedes se aclaren

que los ciudadanos alaveses y como alavesa se lo digo no podemos estar al albur de cambios de gobierno de cambios de partidos en el gobierno vasco

pactos en un determinado momento para ya conocer qué modelo de asistencia sanitaria defienden ustedes en álava dónde se quedan las especialidades qué pasa con los crónicos

está desechado y finalmente la cuestión más importante qué recursos se van a destinar para ese modelo del futuro hospital universitario de álava que ustedes plantean ahora que parece que es nuevo y las diferentes inversiones que ustedes pretenden realizar porque si no vamos a estar como siempre y ya vimos que con ustedes anteriormente

ustedes gobernando durante tantos años se paralizaron en materia sanitaria eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jaunak dauka hitza

una reorganización hospitalaria de estas características quien lo conozca sabe que es un proyecto complejo apasionante y que se está intentando realizar en colaboración con la mayoría de los agentes implicados yo espero que al final nos pase como con el acuerdo con la rioja que vaya de hecho usted después a sacarse la foto al hospital universitario de araba que estará bien

legebiltzarkideok señor consejero eguerdion

el derecho a la salud es universal y no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal eso es algo en lo que creo que coincidimos usted y yo señor consejero pero es que además lo dice también la ley general de salud pública

a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento origen racial

religión convicción u opinión edad discapacidad orientación o identidad sexual

la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública

que hasta el veintidós de julio de este año este precepto se ha cumplido en euskadi pero desde entonces desde el veintidós de julio las personas que no tienen regularizada su situación administrativa carecen de tarjeta sanitaria esto es consecuencia de la orden publicada

que desarrolla el decreto elaborado por el gobierno socialista para eludir el mandato del gobierno central de anular la atención sanitaria a estas personas insisto el decreto publicado por el gobierno socialista había que desarrollarlo

mientras se desarrollaba este decreto euskadi ha seguido prestando la asistencia sanitaria a estas personas como siempre y como antes en medio el gobierno de españa recurrió esta decisión sin que afectara a las prestaciones de este colectivo en euskadi y el gobierno de euskadi

en diciembre dos días antes de que este gobierno tomara posesión por tanto

el que permitía mantener la cobertura del derecho a la salud de forma universal y gratuita no así como ya sabemos el tratamiento del copago

y también podría calificarse así de egoísmo garantizar una asistencia a las personas llegadas de otros lugares aunque carezcan de permisos legales permite evitar o limitar la expansión de enfermedades

padecer estas personas que acabarían derivadas en urgencias o en ingresos hospitalarios más costosos para el sistema sanitario por cierto carecerán de permisos pero eso no es impedimento para que paguen impuestos en fin voy a terminar en la segunda parte espero que me dé usted respuesta a esto muchas gracias

presidenta anderea legebiltzarkideok es que tenía mucho escrito señora roncal vamos a ver

da estabilidad a la atención de las personas sin documentación legal

pero no es más que el desarrollo del decreto ciento catorce barra dos mil doce sobre régimen de las prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud en el ámbito de la comunidad autónoma de euskadi este decreto como conoce se promulgó la pasada legislatura por el anterior ejecutivo vasco

y afortunadamente no suspendido por el tribunal constitucional en lo que respecta

sin permiso legal de residencia pero permítame que le lea de ese decreto perdón de esa orden

lo que afecta a las personas las personas sin documentación legal el decreto exige que cumplan tres requisitos estar empadronadas en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma de euskadi

un año ser persona perceptora de prestaciones económicas integradas en el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión a obtener ingresos inferiores

por cualquier otro título es decir las personas sin permiso legal de residencia tenían derecho a recibir asistencia sanitaria si tenían la tis antes del uno de septiembre del dos mil doce o

se acreditaban de forma simultánea los tres criterios la orden

esta orden no plantea ni regula ni mucho menos restringe la asistencia a las personas que no cumplan los requisitos requeridos por una razón fundamental y es que el decreto ciento catorce barra dos mil doce de la legislatura anterior no da derecho a la asistencia sanitaria de las personas que no cumplan de forma simultánea

las personas en situación administrativa irregular siguieron manteniendo el derecho a la asistencia sanitaria derecho que finalizó o prestación sanitaria que finalizó en el momento en que ustedes aprobaron la orden que desarrollaba el decreto

espero que usted rectifique y que desde aquí la ciudadanía reciba el mensaje de que los políticos defendemos el derecho universal a la salud como un derecho que no tiene restricciones como le he señalado antes ni de origen ni de religión

provisional provisional han visto regulada

exactamente igual que el resto de las personas que vivimos en la comunidad autónoma además

del dos mil doce hasta agosto de dos mil trece hemos resuelto tres mil setenta y ocho solicitudes de aseguramiento

y desde el veintidós de julio que se publicó se han resuelto mil novecientos cuarenta y dos más entiendo

pues hombre si es suyo para una cosa que estamos de acuerdo pero entiéndame no parece lógico ni procedente modificar el artículo de un decreto a las pocas semanas o meses de que el tribunal constitucional

no obstante en la misma línea de pensamiento que creo compartimos desde el pasado lunes hay una instrucción dictada por el director de aseguramiento y contratación para asignar médico de atención primaria a este colectivo

y evitar su atención exclusiva en urgencias eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna eta amaitzeko gai zerrendako

zurea da hitza gracias señora presidenta señora consejera buenos días las juntas
generales de álava aprobaron en pleno una moción que en uno de sus puntos decía lo siguiente

en contra de la privatización de la gestión del agua y haga las modificaciones legales necesarias para impedir la posibilidad de la privatización de esa gestión por parte de los ayuntamientos en la primera parte de este párrafo estoy segura que la compartimos no tengo ninguna duda algunos parece que sí qué cosas y quiero expresar que para el grupo popular el agua no es un bien comercial como lo demás

y por eso estamos en contra de la privatización de la gestión del agua

lo que desconocemos es qué ha hecho como dice

petición manifestarse en contra y es lo que le preguntamos entre otros

iniciativa fue su partido el partido nacionalista vasco que usted representa en esta cámara y la segunda parte del punto dice qué modificaciones legales piensa ejecutar para impedir la posibilidad de la privatización

y cómo va a dar usted cumplimiento a esta iniciativa

legebiltzarkideok señora lópez de ocariz el gobierno vasco y también la mayoría de las administraciones públicas de la comunidad autónoma del país vasco han considerado siempre que el agua el recurso natural por excelencia ha de ser considerado como un bien público al que toda la ciudadanía tiene derecho a acceder

entiende este gobierno que así ha de seguir siendo la experiencia en la gestión del agua al menos la de los entes gestores con suficiente masa crítica es francamente buena

que la contribución de la ciudadanía se destine exclusivamente a la excelencia en los servicios de la gestión pública del agua

tampoco superávit más allá del necesario como remanente para invertir en adicionales necesidades en la mejora o mantenimiento del servicio en cuanto al marco normativo

que hasta ahora ha servido para hacer prevalecer la gestión pública del agua no obstante no descartamos la posibilidad de analizar eventuales refuerzos en esta línea de defensa de lo público

efectivamente señora consejera usted con la normativa que existe en este momento poca capacidad tiene para cumplir mandato de las juntas generales otra cosa es que ustedes modifiquen la ley de territorios históricos o pretendan modificarlo y cambiemos las competencias o la

régimen local que ustedes creo que de momento no la pueden modificar y estas son las consecuencias de quien prioriza los intereses político mediáticos por encima de intereses de las personas y

nos parece que es importante hablar de cómo está aplicándose directiva marco del agua y cómo se va a dar cumplimiento

y sería interesante saber cuál es el grado de implantación de la directiva marco

también sería interesante cómo se aplica esta medida en las entidades locales y si tienen ustedes algún servicio

para que esta directiva marco sea de pleno cumplimiento en el año dos mil quince eskerrik asko lópez de ocariz andrea eta amaitzeko

señora lópez de ocariz me ha dejado desconcertada se lo aseguro

estábamos en una pregunta sobre privatización del agua y ahora me hace otra diferente sobre la directiva marco del agua y las medidas de recuperación de costes y los

para las administraciones locales o para los entes gestores del agua en todo eso como usted sabe bien

y me voy a centrar en volverle a referir alguna concreción sobre lo que ha dicho de las cuestiones legales

que es la que marca las competencias como usted bien sabe y deja la competencia de saneamiento y abastecimiento por tanto la gestión del agua en manos locales como la ley de contratos que es la que marca

por tanto las modificaciones que haya que hacer sobre esas leyes básicas habrá que plantearlas en el congreso de los diputados y por otra parte también decirle que no vemos con preocupación la privatización de la gestión del agua en la comunidad autónoma excepto en un caso

en el único lugar donde se ha planteado iniciativas estudios tendentes

ambisa es el único ente que afortunadamente ha ido ya para atrás pero es el único ente en el que